sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señoras y señores consejeros señor lehendakari upyd va a votar en contra de este proyecto de presupuestos porque seguimos pensado que hay alternativa política y alternativa

al partido nacionalista vasco seguimos pensando a día de hoy que hay alternativa política al partido nacionalista vasco y alternativa presupuestaria al partido

nuestras enmiendas parciales y nuestros argumentos demuestran perfectamente el partido nacionalista vasco

la idea de que no había alternativa ha venido a decir

y esta tiene que ser la distribución de esos recursos disponibles nosotros tenemos que decir muy claramente que esto es radicalmente falso y que

alternativa como volveremos a demostrar eran posibles por lo tanto unos presupuestos más sociales y más atentos a las necesidades de los ciudadanos eran posibles unos presupuestos más atentos y más dispuestos y más disponibles a la creación de empleo digno

de calidad este es un proyecto de presupuestos que consolida recortes sociales que no prioriza correctamente el uso del dinero público que obvia la situación de precariedad y de pobreza en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos no sirve para incentivar la actividad económica y crear empleo estable digno y de calidad este es un proyecto de presupuestos que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía vasca y que queda lejos

de presupuestos tiene su origen y hay que recordarlo en el pacto político suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi hace algo más de un año un pacto político que no tenía y no tiene otro objetivo que anteponer sus intereses

intereses electorales de cada uno de los partidos políticos a los intereses de los ciudadanos un pacto político que no tenía y no tiene otro objetivo que blindar sus ámbitos de poder a día de hoy ya podemos decir muy claramente que el pacto

entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi es un clarísimo fracaso también podemos decir que los presupuestos del ejercicio dos mil catorce

fracaso y tenemos que decir que el proyecto de presupuestos del año dos mil quince incide en los errores cuando se toman las mismas decisiones

los mismos resultados y en lugar de impulsar las reformas que euskadi necesita lo que se pretende lo que se propone es dejar las cosas básicamente como están y cuando esto se hace la conclusión a la que nosotros llegamos es que los resultados van a ser básicamente y obviamente no podemos olvidar cuáles son los intereses generales de la ciudadanía vasca y la situación de precariedad y de pobreza en la que se encuentran miles y miles de ciudadanos este proyecto venía cerrado el proceso de negociación

y únicamente ha servido para el trapicheo orquestado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi en forma de enmiendas parciales vergonzantes y vergonzosas en un ejercicio

de antipolítica este pacto político que da origen a este proyecto de presupuestos ha fallado clamorosamente porque a ambos partidos al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi los intereses de la ciudadanía

ez dituelako konpondu podemos recordar qué es lo que decía

algo más de un año cuando se firmaba ese pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi decía el señor

empieza hoy hay un antes y un después de la firma del acuerdo partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi es un documento de gran valía

marca la senda para la modernización de euskadi son propuestas nítidas y concretas que van a la raíz de los problemas se trata de un acuerdo que va a tener un gran impacto y estamos

ante la mejor noticia política en mucho tiempo hoy sabemos cuáles son los resultados de ese pacto político de ese pacto presupuestario entre el partido nacionalista vasco

de euskadi que era lo que yo decía hace aproximadamente quince meses en relación a ese pacto yo decía que es un pacto para defender

partidarios y yo decía que no es un pacto para modernizar euskadi ni para resolver los problemas de los ciudadanos sino que es un pacto para dejar las cosas básicamente como están o al menos para dejar como están muchas de las cosas cambiarse y yo decía que no hay ambición ni espíritu transformador y seguimos en lo mismo no hay ambición ni espíritu transformador en este proyecto de presupuestos que ambos partidos políticos nos han presentado y a los hechos me remito a día de hoy casi ciento setenta mil vascos siguen en situación

vascos el ochenta y cuatro por ciento de la ciudadanía vasca dice sentir los efectos de la crisis

ciudadanos en euskadi viven en la exclusión social

de vulnerabilidad social es decir casi un millón de personas que corren el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social se ha duplicado en un año

por la falta de recursos materiales y se ha incrementado la desigualdad aquella parte de la población definida como completo bienestar

al treinta y ocho coma siete por ciento del dos mil catorce mientras que aquella parte de la población definida como bienestar casi completo se ha reducido de un cuarenta coma cinco por ciento

y el resto de la población donde se encuentran los más necesitados se ha incrementado del veintisiete coma cinco por ciento al treinta y uno coma dos por ciento ciertos datos claros que demuestran que la desigualdad se ha incrementado en los últimos tiempos y ya digo que este proyecto de presupuestos sigue en la misma senda seis de cada diez parados vascos lleva un año sin empleo cuatro de cada diez parados vascos llevan años sin empleo el cuarenta por ciento de nuestros jóvenes se encuentra en situación de desempleo y sin expectativas de encontrar un empleo digno en euskadi salvo eso sí que consideremos empleo digno cobrar quinientos euros al mes por ocho horas de trabajo diarias el doce por ciento de los vascos no llega

el veintidós por ciento de las familias numerosas tira de ahorros o se endeuda para acabar el mes más de la mitad de los hogares vascos tiene dificultades para pagar los gastos básicos un once por ciento más que en el ejercicio dos mil doce la pobreza energética afectaba en euskadi en dos mil doce al cuatro por ciento de los hogares ochenta y siete mil personas a día de hoy la cifra supera ya los

ciudadanos y además se ha consolidado una nueva clase social personas que trabajan pero no llegan obviamente de todo esto es responsable el gobierno vasco de todo esto es responsable el partido nacionalista vasco

que el gobierno vasco no ha resuelto y que este proyecto no enfrenta se ha incrementado la pobreza se ha incrementado la precariedad laboral y se ha incrementado la desigualdad estos son los datos que ignora omite y desprecia el gobierno vasco estos son los datos

insensible el gobierno vasco estos son los datos que este proyecto de presupuestos no enfrenta estos son los datos que este gobierno no solo no resuelve

ha agravado durante los últimos meses estos son los datos que este proyecto de presupuestos ni afronta ni va a resolver y digo que no va a resolver porque las mismas medidas suelen provocar los mismos resultados por esto digo que este pacto político y este pacto presupuestario

inmenso fracaso porque no ha servido para resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía vasca en lugar de impulsar las reformas que euskadi sigue necesitando lo que se hace es más de lo mismo y ya digo que cuando se toman las mismas decisiones que en el pasado

y dejar todo como está evidentemente los resultados van a ser los mismos además se consolidan

y se limita el estado del bienestar mientras se destinan millónes de euros de dinero público a actuaciones innecesarias o no prioritarias

mientras que en dos mil nueve suponían el cinco coma tres por ciento

mientras que en dos mil nueve suponían el cuatro coma tres por ciento a la agencia vasca de cooperación al desarrollo se destinan cuarenta millónes de euros lejos de los cincuenta coma seis millónes de euros de dos mil doce por lo que se incumple

de la ley de cooperación al desarrollo se mantienen

se mantienen las embajadas prioritarias para el nacionalismo vasco pero no para upyd presupuestadas en dos coma seis millónes

en dos mil doce los sesenta y cinco millónes de euros se mantiene en dos mil quince en la misma cuantía que en dos mil catorce es decir treinta y siete millónes

y de nuestro futuro sigue siendo claramente insuficiente lo mismo podemos decir en relación a las becas a la innovación a la competitividad

de nuestras empresas a los centros tecnológicos al comercio al turismo no se hace el esfuerzo necesario mientras se mantiene gasto innecesario superfluo e improductivo las ayudas de emergencia social se incrementan respecto

de veintidós millónes de euros cuantía insuficiente para cubrir toda la demanda además

prorroga por cuarto año consecutivo el recorte del siete por ciento en las prestaciones socialesque el gobierno socialista validó las cuantías presupuestadas

se presupuestan insuficientemente treinta millónes más un incremento mínimo acordado con el partido socialista de euskadi cuantías también que serán

y que no cubrirán la demanda real el gobierno vasco tampoco impulsa ni política ni presupuestariamente la vivienda pública

cantidades millónarias a asuntos que no son en absoluto prioritarios urgentes ni necesarios podemos citar el caso de san mamés barria se presupuestan diez millónes más para hacer frente

tres coma tres millónes en este proyecto de presupuestos además no se hace el esfuerzo necesario en lo que se refiere a infraestructuras y obras en centro educativos ni en lo que se refiere al trilingüismo

del profesorado mientras se destinan inmensas cantidades de dinero público a la euskaldunización o a la e i te be euskaldunización más de ciento diez millónes de euros y cosa parecida a e i te be la aportación a la upv también es insuficiente y no los niveles de dos mil doce por lo tanto se lastran asuntos que son primordiales para la sociedad vasca asuntos que son prioritarios para el conjunto

a asuntos que no son en absoluto urgentes ni prioritarios no hay dinero suficiente se nos dice para la educación para la sanidad

para las ayudas de emergencia social para las ayudas a la conciliación pero sí para mantener partidas innecesarias no hay dinero suficiente para poner en marcha

para poner en marcha un plan contra la pobreza infantil o para poner en marcha medidas contra la pobreza energética pero sí los hay al parecer sí hay dinero suficiente para cubrir los asuntos propios del partido socialista de euskadi para sus municipios afines en un ejercicio vergonzoso de anti política sí hay dinero al parecer sí ha habido dinero sí se ha encontrado dinero

para los asuntos propios del partido socialista de euskadi no había para lo importante

para los municipios del partido socialista de euskadi para sus bidegorris para sus fundaciones para sus asociaciones amigas para sus centros museos locales clubes deportivos para sus pasarelas peatonales para sus campos de fútbol para sus zonas verdes y para financiar

posible candidato a la diputación foral del partido socialista de euskadi esta es la forma que tienen el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

a los problemas sociales de la ciudadanía a través del clientelismo y la anti política el partido nacionalista vasco presenta un proyecto presupuestario insuficiente para atender

que están sufriendo todos los días la crisis pero eso sí se saca de la chistera unos cuantos millónes más

los asuntos propios del partido socialista de euskadi nada que ver con las enmiendas parciales que ha venido defendiendo y que planteó en su momento upyd nada que ver lo nuestro con la anti política que han ejercido algunos partidos políticos de esta cámara nosotros sí que hemos tratado de

intentar mejorar la vida de los ciudadanos vascos de ahí que con nuestras enmiendas proponíamos incrementos de ciento trece millónes de euros para la educación de noventa millónes de euros para el departamento de desarrollo económico y competitividad y cuarenta y uno coma tres millónes de euros para el departamento de salud o de casi cuarenta millónes el departamento de empleo y políticas sociales con nuestras enmiendas parciales hemos reivindicado también un incremento de diez millónes de euros para las ayudas

a la conciliación once coma ocho millónes de euros más para la cooperación al desarrollo

a la pobreza energética cinco coma cuatro millónes de euros para vivienda en alquiler quince coma seis millónes de euros más para la upv

más i que tanto la sociedad vasca nosotros sí que hemos intentado

observar y atender las necesidades reales de la ciudadanía vasca horregatik eta horretarako gure zuzenketak ongizatea

herritarren arazoak konpontzen laguntzeko también hemos propuesto a través de nuestras enmiendas parciales

organismos que consideramos que no sirven a la sociedad vasca que están de más que sobran que no cumplen sus objetivos y que por lo tanto a través de nuestras enmiendas planteábamos su supresión

el consejo superior de cooperativas la agencia vasca de protección de datos o euskalmet organismos claramente superfluos que nos suponen diez

en lugar de destinar los recursos a lo realmente importante insisto se mantiene gasto que es absolutamente superfluo e innecesario

se nos dice que no hay dinero para las ayudas a la conciliación se nos dice que no destinarse más recursos a la educación que no pueden destinarse más recursos a la salud que no pueden destinarse más recursos

que no pueden destinarse más recursos para la creación de empleo y sin embargo se mantiene gasto absolutamente superfluo e innecesario

de presupuestos continuista conservador y defensivo donde no se recogen novedades relevantes es básicamente más de lo mismo el problema es que hay una buena parte de la sociedad

que hace dos años y que está peor que hace un año y a esa parte de la sociedad es la que prioritariamente deberían atender

el gobierno vasco omite esta realidad da la espalda a miles de ciudadanos que están sufriendo en sus carnes la crisis el desempleo

todos los días del año es un proyecto de presupuestos que consolida recortes sociales que no alcanza a cubrir las necesidades reales

que no distribuye el destino del dinero público de manera acertada y que no sirve para incentivar la actividad económica y crear empleo

y de calidad el gobierno vasco el partido nacionalista vasco obvia las reformas modernizadoras que euskadi necesita y equivoca las prioridades mientras se consolidan recortes en el estado del bienestar y se mantiene ante el incremento de la pobreza y la exclusión social destina cantidades millónarias a entes superfluos o administraciones innecesarias obviando que los recursos públicos son limitados en conclusión

en contra de este proyecto de presupuestos porque seguimos pensando que había y que sigue habiendo alternativa política al partido nacionalista vasco que había y sigue habiendo

al partido nacionalista vasco los presupuestos del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi consolidan recortes y ajustes y están plagados de duplicidades ineficiencias organismos superfluos gastos absurdos y gastos

son unos presupuestos claramente insensibles ante la realidad social ante la realidad personal ante la realidad particular que sufren

de presupuestos que trata de resolver los problemas que puedan tener el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi pero que no resuelve y que no atiende la realidad social que no atienden a en la que se encuentran miles y miles de ciudadanos vascos víctimas como digo de la precariedad del desempleo de la desigualdad y de la pobreza
y por todo esto vamos a votar en contra de este proyecto de presupuestos eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

este año parece que también va a tener este gobierno presupuestos ahora tampoco podríamos hablar de estabilidad presupuestaria

porque cuando los presupuestos van a responder a un acuerdo que debe ser bastante vergonzante para que los que lo acuerdan tampoco voten

eso significa que el acuerdo o no es muy estable o ustedes sabrán exactamente

lo dijimos el primer día son unos presupuestos

los gobiernos cuando hay escasez de recursos demuestran que son gobiernos demuestran que gobiernan porque toman medidas toman decisiones y priorizan el gasto yo solo le voy a poner un ejemplo de estos presupuestos que es bastante simple y bastante sencillo porque además lo explicó bastante bien el consejero de economía cuando compareció en el parlamento para explicar estos presupuestos

y a qué se destinan los cuatrocientos y pico millónes más pues se destinan al pago de la deuda

ninguno ninguno cero y cuando estamos

de situación económica en la que estamos que en fin que no estamos para tirar cohetes de ninguna forma y por eso el año pasado ofrecimos el acuerdo de estabilidad no solo en esta institución en todas las instituciones porque es bueno

dar credibilidad al resto de los agentes económicos sobre todo a los que tienen que invertir y crear empleo de verdad pues bueno este año ustedes han apostado porque eso

que es mejor restar en vez de sumar y nos encontramos hoy en el último trámite de la aprobación de unos presupuestos en el que responde a un acuerdo pero un acuerdo que debe ser tan vergonzante que no todos van a votar lo mismo de los que han acordado este presupuesto supongo que eso lo explicarán ellos pero es evidente que sí había alternativa a lo que se ha hecho y a lo que se ha planteado y había alternativa en la misma dirección que se hizo en el dos mil catorce

que modifican más de doscientos millónes de euros el presupuesto que ustedes nos han presentado yo por explicar algunas cosas que nos parece que creo que hay que dejarlas claras desde el principio porque no es inocuo apostar por unas políticas o por otras

recortar las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral y luego decir que tenemos problemas

de que somos una población más envejecida y lo que hacemos es precisamente las políticas que van dirigidas a incrementar esas partidas o a que esta sociedad

y eso sí es una decisión del gobierno y esa decisión la hemos visto en este ejercicio hace pocos meses y vemos que en el presupuesto persiste y se insiste en la misma no es lo mismo que se nos presente teóricamente empezamos a salir de la crisis

empezamos a tener más ingresos que no responden a la subida de impuestos por mucho que el representante socialista se empeñe en decir que aquel famoso pacto fiscal lo que ha hecho es que gracias a eso tengamos más ingresos

del crecimiento que tenemos que es de la demanda interna hay alguna medida para favorecer eso la demanda interna que siga creciendo no no hay ninguna lo contrario hay que mantener los impuestos altos y que la gente en fin digamos pueda consumir menos tirar menos de la economía eso es lo que traen nuestros presupuestos no traen ni prevén ni siquiera sepueden imaginar

no no hay que tener más dinero en el gobierno para gastarlo en sí mismo y en sus gastos no en los gastos

nosotros hemos presentado varias enmiendas que evidentemente lo que incrementan son las partidas destinadas a la inversión a la inversión real decía que no es presentable y no es presentable que cuando el presupuesto crece cuando la economía empieza a crecer el gobierno

que la inversión lo que fomenta el empleo crezca cero y que incluso la inversión prevista la directa del gobierno

no es normal no es normal que el pnv en el congreso de los diputados esté exigiendo

y no se aplican el cuento incluso nos dicen no vamos a parar las obras del metro porque claro no hay dinero no sí hay dinero lo que pasa es que hay que priorizarlo

sí hay más dinero para otras cosas para el euskera y para otras cosas sí que hay dinero

pues algo lo estaremos haciendo muy mal y encima no nos sirven para nada señor lehendakari ahí nos podemos ahorrar un par de millónes de euros solo en esas medidas por qué no aplican

y no lo aplican aquí por qué los discursos que hacen en madrid de exigencia de inversión pública aquí no se aplican

que en madrid no importa la deuda que se tenga hay que invertir y mantener la inversión evidentemente será contra otras partidas y ustedes aquí

porque esta es una pregunta que el partido nacionalista vasco y el lehendakari debería de responder por qué se dice una cosa y se hace la contraria

porque nosotros sí estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen en madrid que hay que hacer y de hecho lo hacemos

que la de este gobierno pero es que este gobierno ni siquiera se aprovecha de las medidas

con la prima de riesgo a más de seiscientos que a poco más de cien

de los más de cuatrocientos millónes casi doscientos van a ir al pago de la deuda pero es que si no serían más de doscientos y ese ahorro que se está produciendo ahí a qué se aplica

nosotros no vemos en este presupuesto que se aplique a fomentar los emprendedores ayudar a las empresas no lo vemos y cuando vemos las partidas del dos mil catorce qué vemos que no se ejecutan vemos que no se ejecutan

no sería contra el gasto corriente nosotros sí creemos que el partido nacionalista vasco debería tener una idea de país de qué país quiere yo no sé si ustedes quieren un país de subvencionados de personas mayores seguimos siendo los mismos que hacen veinte treinta años treinta años más viejos pero los mismos dos millónes

cuál es el planteamiento de este gobierno este el planteamiento de este gobierno es que a pesar de tener las competencias en casi todo

el presupuesto de este gobierno es que la inversión que va a hacer es la misma prácticamente este año que la del gobierno de españa

y si no se hiciese la y aquí qué inversión habría

al que el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco nos quiere llevar

qué medidas se plantean aquí para corregir las previsiones del gobierno las del eustat

y que cada vez vamos a ser más mayores cada vez vamos a tener menos ingresos y cada vez vamos a tener más gastos qué medidas se están planteando en este presupuesto para hacer país como dicen ustedes o como les gusta a ustedes

pero cómo se hace país haciendo qué nada porque es

en este presupuesto miren nosotros entendemos

tomar decisiones entendemos que es complicado que haya que cerrar determinadas sociedades que no aportan nada a los ciudadanos entendemos que es complicado pero gobernar

es tomar decisiones decisiones que afectan a los ciudadanos a los ciudadanos no al partido del gobierno o al gobierno que también pero básicamente decisiones

pues mire pues nosotros lo que vemos en estos presupuestos es la apuesta del gobierno por la nada pero no sé si eso responde al pacto con el partido socialista o es motu propio del gobierno apuesta por la nada ninguna medida ya nos decía el consejero

hombre expansivos en cuanto a lo que se entiende de expansivo de fomento de la economía expansivos en cuanto a la inversión al fomento del empleo evidentemente no lo son

ahora expansivos en cuanto al crecimiento del gasto corriente claro cuatrocientos euros más en ese sentido sí que son expansivos

no pensamos aportar nada porque a nada que aportáramos

solo acompañando un poco las medidas de los demás o este gobierno quiere ser un gobierno que subvencione

porque el problema aquí señor lehendakari es de verdad tienen ustedes un modelo de país eskerrik asko damborenea jauna

que teníamos disposición de intentar llegar a acuerdos para

que veíamos confirmada con los datos del informe sobre la pobreza con los propios datos que se arrojaron en este pleno y sin embargo

de este gobierno la respuesta que nos ha lanzado y que ha lanzado a la sociedad es que va a seguir la misma senda de presupuestos que ha venido realizando los años anteriores obviando que en los años anteriores ha aumentado la bolsa de pobreza en nuestra sociedad obviando

de dar con una sociedad más justa más redistributiva más solidaria y no confundamos la caridad con la solidaridad y esa fotografía es una fotografía cruel es una fotografía muy dura es una fotografía para lo único

es un acuerdo continuista un acuerdo a nuestro juicio muy barato

que no da solución a los verdaderos problemas de esta sociedad y sobre todo y fundamentalmente no da solución a los problemas de la mayoría de las personas que lo están pasando terriblemente

vemos que en protección social siguen quedándose fuera de la misma muchísimas personas vemos que la activación económica y el empleo se sustancia en dar dinero a empresas

sean contratos de calidad sean contratos justos sin exigirles nada a cambio vemos

vemos que la sanidad que la educación siguen sufriendo reveses importantes en un momento en el que lo que deberíamos hacer es garantizar mínimos de cohesión social

realmente nadie se quedara fuera de esta recuperación económica que algunos anuncian pero que poca gente ve

y lo mismo podríamos decir de esas áreas mal llamadas transversales que serían vertebrales en cualquier presupuesto lo que tiene que ver con la igualdad lo que tiene que ver con la cooperación lo que tiene que ver

que siguen siendo denostadas cuando no arrinconadas en estos presupuestos es por tanto una lectura de presupuestos que arroja por la borda a decenas de miles de personas y no lo dice solo euskal herria bildu el propio consejo económico y social habla de esto habla de cómo crece la brecha de la desigualdad de cómo crecen las diferencias

con los niveles actuales de protección social porque hay diferentes maneras

una quitándola drásticamente otra diciendo que se han acabado los dineros pero que no lo quitas como las ayudas de conciliación pero así incentivando su desánimo y por tanto que pidan las ayudas y otra directamente es endurecer las condiciones de acceso como ya se hizo en la anterior legislatura y como el partido popular quisiera hacer

para que se cree una verdadera sima una verdadera barrera entre una parte de la sociedad los que menos tienen

de la misma se arroja por la borda a decenas de miles de personas

un dogma como si fuera un dogma de fe que no hay vida al margen de este sistema que no hay vida al margen de las exigencias y las estrecheces que nos imponen los mercados también

este gobierno tiene como uno de sus lemas principales pertsonak helburu entiendo que cuando hicieron ese lema querían hacer ver a la ciudadanía que la centralidad de su acción política iba a ser el bienestar de las persona

bien pertsonak helburu también puede situarlas como objetivos como objetivos de una política que parece que está preparada para abatirlos para lanzarles

por desgracia porque no creo que fuera el objetivo y lo digo con sinceridad eso

que este gobierno está siendo incapaz está siendo ineficaz a la hora de solucionar sus problemas lo decían estudios recientes de la semana pasada

buena parte de la ciudadanía desde hace mucho tiempo lo dice la calle en sus continuas movilizaciones

se está yendo por una dirección equivocada se está percutiendo siempre en una línea de acción política a través de presupuestos que lleva un hilo continuista que no arregla los problemas y sin embargo siguen ustedes

hablaba de la protección social como uno de los elementos destacables de este presupuesto que hoy nos presentan y cuál es la realidad se ha señalado antes por los dos intervinientes

la población que vive en la comunidad autónoma vasca se encuentra en riesgo de pobreza

ciudadanos o ciudadanas vascas corre el riesgo de caer en la pobreza y eso no lo han solucionado sus políticas en lo que llevamos de legislatura en este ecuador de legislatura

dar la vuelta a esa situación porque su acción de gobierno no es diferente a las acciones de gobierno que se llevan en otros lugares como en madrid por ejemplo es blindar los intereses del mercado denostando las necesidades de las personas hay más

que están ya en la exclusión que viven ya en la exclusión en la pobreza severa hay

sí creemos en un poder públicofuerte sí creemos en la intervención de la economía a través del sector público para corregir los desequilibrios cuando no para acabar con esos desequilibrios y con esos privilegios vemos que hay más de ciento sesenta y cinco mil parados

el aplauso hacia la acción de este gobierno y seguimos viendo que la pensión de las mujeres es sensiblemente menor que la pensión de los hombres setecientos sesenta y nueve euros de media cobran las mujeres

una sociedad desestructurada una sociedad donde la fractura social aumenta y una sociedad profundamente desigual porque no es capaz de considerar como iguales a quienes en puridad

y qué es lo que proponen estos presupuestos seguir por la misma senda

dura que nos sitúa ante una realidad que seguramente nadie quisiera tener delante que nadie quisiera ver y por eso plantean

planteamos que se aumente los recursos para la renta de garantía de ingresos en setenta millónes de euros más porque señalaban hace escasos días algunos medios de comunicación que muchos de los nuevos contratos que se hacen en la comunidad autónoma vasca de esos

tiene que ser complementados con la renta de garantía de ingresos por lo tanto no se trata ya siquiera

que no tiene ya derecho de desempleo tenga que recurrir a la renta de garantía de ingresos para poder vivir

para que ese mal llamado salario que parece un diezmo de esclavitud tenga

y lo mismo vemos con las ayudas de emergencia social no pedimos dinero porque sí no pedimos incrementar en once millónes de euros más

por establecer un techo o un límite más alto lo pedimos porque eso es lo que se necesitó ya el año pasado no somos capaces ni siquiera de aventurarnos en cual puede ser la previsión de nuevas necesidades simplemente décimos que se dote a las ayudas de emergencia social con la cantidad que fue necesaria emplear el año pasado y que no caiga sobre los ayuntamientos

pudiera llevar a cabo este gobierno porque como se ha recordado también hasta la saciedad

creemos que la solidaridad la justicia social tendría que encontrar cumplida satisfacción en diez mil seiscientos treinta y nueve millónes de euros

pedimos treinta millónes de euros más para las ayudas de conciliación porque son necesarias porque no nos vale que nos digan que la partida no ha desaparecido sino que los gastos o que los fondos se han acabado

desincentivar que vuelvan a pedirla porque ustedes y nosotros sabemos

no plantea ni cree que vaya a tener posibilidad de acceso al año que viene y que esa misma carta mute en una carta de aceptación

y dé por perdida también la necesidad o la posibilidad de optar a una ayuda para equilibrar sus cuentas familiares

del repago hablamos mucho de cómo nuestros mayores están siendo el colchón de la sociedad cómo están consiguiendo que las grietas y las brechas de fractura social no sean aún mayores

no es capaz de aumentar lo necesario y por eso planteamos siete millónes más las ayudas para el repago que es otro de los males que afectan a los ya bastante maltrechos pensionistas y sin embargo

y frente a la negativa a las enmiendas que les hemos trasladado se nos habla de crecimiento económico

para quién para quién nos preguntamos para quién ya está realmente mal para quién no ve en este gobierno respuesta a sus problemas el debate es muy sencillo y es verdad y no lo voy a ocultar que hay un choque de modelos y luego

nos vamos a las latitudes del mundo que ustedes quieran para ejemplificar los choques de modelos

estamos en un momento en un contexto en el que hay que elegir o hacemos políticas para la reproducción del capital o hacemos políticas para garantizar la sostenibilidad de la vida digna

es garantizar los recursos para todas las personas absolutamente todas las personas sin embargo garantizar la reproducción del capital es optar por una línea continuista

ya se encargará porque lo necesita de generar empleo y de generar si acaso bienestar

a los cambios del mercado de trabajo y es una lectura que no atiende a las necesidades del sistema capitalista en la actualidad

y sin embargo ustedes percuten en esa dirección seguimos pese a todo ofreciéndoles nuestra mano tendida para que apuesten por la sostenibilidad de la vida digna frente a la reproducción del capital una reproducción del capital que a veces

como en estos años de estafa llamada crisis que permite que lo que unos han gastado especulando lo paguemos todos sufriendo y todas sufriendo

habla de estas cuestiones dice que el sistema de garantía de ingresos llega en dos mil catorce a un setenta y dos coma nueve de la población no está mal hay otra manera de leer estos datos

de protección social no la encuentra en las políticas de este gobierno

es bastante dramático el dato también dice

no consiguen salir de la situación de pobreza no consiguen salir pese a las políticas activas de empleo

a continuación entiendo esateko hitzez hitz beraz

seguramente hoy volverán a decirnos que nuestra situación es sensiblemente mejor que la del resto del estado español

que poca lectura de gobierno podemos tener en otras comunidades autónomas porque renunciamos a tenerla nuestro proyecto está aquí porque nace aquí y hacia aquí mira y se orienta en euskal herria pero simplemente señalarles o sugerirles

que mientras nuestra tasa de desempleo juvenil es del cuarenta y seis por ciento

en europa en la eurozona es del veintinueve coma ocho o que miremos también la presión fiscal que mientras aquí es del treinta y uno coma seis en europa es del treinta y ocho coma cuatro

con la que debiéramos compararnos no tanto con la del estado español que bastante tiene con los gobiernos que tiene sufrir y padecer sin embargo la realidad

es una realidad que arroja más oscuros que claros

a la difícil situación que cada día atraviesan más y más personas trabajadores y trabajadoras y también empresarios y empresarias manifestazioa izan zen duela

alestis arkema candy condesa corrugados azpeitia

lanpostuak sortuko dituena lanpostuak baldintza duinetan puestos de trabajo en condiciones dignas y no

sus ayudas porque en realidad lo que este gobierno y no es el único el anterior también ha venido realizando durante años

ha sido comprar boletos subvencionales a algunas empresas para ver si les tocaba

pero el gordo siempre les sortea porque no hace falta ser demasiado inteligentes para saber que las posibilidades de que te toque la lotería son realmente escasas por eso planteamos enmiendas que hablaban de la necesidad de ciento quince millónes más para crear un fondo de empleo

a realidades y necesidades que hoy en día no se tienen en cuenta a la hora de entregar ayudas como la generación de empleo digno y con derechos hablábamos

para paliar la pérdida de poder adquisitivo hablábamos de diez millónes de euros más para actualizar las pensiones a aquellos que mantienen todavía ciertos niveles de cohesión

y mejorar así su funcionamiento y su calidad asistencial hablábamos y hablamos de dos coma cuatro millónes de euros más en educación para generar también más empleo público

que no invierte en educación es una sociedad condenada al fracaso pero también teníamos enmiendas

de definir a áreas importantes en lo que tiene que ver con el dibujo que se hacer una sociedad como la cooperación al desarrollo

para la cooperación al desarrollo diez millónes de euros más para paliar los recortes en materia de igualdad tres coma cinco millónes de euros más para reducir las tasas actuales de las haurreskolas que están dejando a mucha gente sin poder permitirse el lujo de acceder a ellas porque no pueden costear lo que en la actualidad ya valen y hablábamos también

para incrementar las partidas de ayuda al euskera para poder llegar así

menos dinero destina al euskera de los últimos seis años no llega al cero coma setenta y seis por ciento creo recordar

no vamos a hacer como hacen otras formaciones políticas nosotros no vamos a criticar las ayudas al euskera para hablar de las necesidades de la gente porque creemos que el país también hay que vertebrarlo

de la defensa de su propia identidad de su propia lengua y es curioso que se hagan críticas a lo que se invierte en euskera por parte de aquellos que no tienen reparos en otros lugares en invertir en defensa en invertir en munición y en armas eta aurrekontuen eztabaidaren puntu honetara iritsita gure taldeak uste du

en todo este debate presupuestario y hoy lo vamos a volver a ser dijimos que ante una situación de emergencia de excepcionalidad era necesario

y que euskal herria bildu siendo consciente de que defiende un modelo muy diferente al que defienden ustedes iba a saber anteponer los intereses generales de la ciudadanía

tienen la oportunidad de poder recoger esa oportunidad

es una oportunidad que no se basa siquiera en exigencias interesadas que se basa en todas estas enmiendas que obedecen a acuerdos parlamentarios

han venido avalados con sus votos hoy tienen la oportunidad de votar a favor de estas enmiendas no vamos a ser nosotros y nosotras quienes les impidamos hacerlo pidiendo el voto unido y no separado de las mismas pídanlo si así lo desean pidan el voto separado para enmiendas que tienen que ver con la sanidad con el oncológico

todo esto ha sido votado mayoritariamente por este parlamento hay quien dice que este parlamento es el templo de la palabra que en este parlamento cabe todo que a este parlamento se le debe máximo respeto no lo vamos a poner nosotros en duda

no lo pongan ustedes votando hoy unos presupuestos que van en contra de acuerdos parlamentarios de decisiones aprobadas por mayoría en este parlamento porque son decisiones que no favorecen a euskal herria bildu que favorecen al conjunto de la ciudadanía

no queremos unos presupuestos caritativos queremos unos presupuestos solidarios y queremos que esta cámara tenga sentido y también nos gustaría pero sabemos que eso va a tener que ser para la próxima carta al olentzero como decía el presidente del euzkadi buru batzar

un camino de proceso constituyente vasco que no nos sometiera a acuerdos imposibles con madrid que no sometiera a este pueblo a seguir los dictados de un estado que se muestra absolutamente dócil y servil con los poderosos e inflexible y cruel

esperemos que algún día más pronto que tarde sea posible recorrer ese camino esa euskal bidea que nos permita recuperar todas las capacidades todas las herramientas para poder decidir sobre todo aquí para poder decidir sobre todas las cosas y decidir aquí y para finalizar sí les haría una petición en nombre de mi grupo esta no tiene que ver con el sentido de sus votos es casi un deseo será por los tiempos navideños sí les pediría que para el próximo curso

o si al menos este gobierno no es capaz de solucionar los problemas de la ciudadanía del conjunto de la ciudadanía que por lo menos con nuestra acción parlamentaria y con la acción de gobierno no los agravemos aún más porque hay muchas maneras de infligir dolor a los ciudadanos y ciudadanos y los presupuestos sin son injustos es una de ellas algo parecido señalaba bertolt brecht en un poema

pueden quitarte el pan pueden no curarte de una enfermedad pueden meterte en una mala vivienda pueden empujarte hasta el suicidio pueden torturarte

lo triste es que solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestra sociedad besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

se siente usted cómodo porque evidentemente la transformación

arrojo es lo que tiene usted para venir a reclamar al partido nacionalista vasco

el camino de la euskal bidea cuando es lo que hemos hecho cuando es lo que hemos hecho políticamente eta gero aurrekontuetan sartuta pertsona ardatz

y el más social de los posibles con diez mil seiscientos treinta y nueve millónes de euros

ese es el propósito y para lo que nuestro grupo parlamentario da apoyo político al gobierno vasco y ese es el objetivo único del partido nacionalista vasco

el carácter pactista del pnv está

y nosotros nuestro grupo parlamentario y el gobierno saben perfectamente

que no tenemos mayoría suficiente para poder seguir adelante y es que además estamos plenamente convencidas estamos plenamente convencidos de que independientemente de que lo tuviéramos o no deberíamos buscar más apoyos sociales más consenso político

estuviera legitimado sí matute hace usted gestos en el sentido de y por qué y por qué no ese acuerdo se ha extendido a otras formaciones políticas por qué si realmente ustedes buscan ese acuerdo con otras formaciones más apoyo político más apoyo social más consenso no lo han conseguido

aprovechar para agradecer al partido socialista la disposición para el acuerdo que han mostrado porque el presupuesto

se aprobará gracias al acuerdo político al acuerdo presupuestario entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y quiero especialmente agradecer también

en el acuerdo del año pasado porque es eso lo que ha facilitado lo que ha facilitado que este año vuelva a convalidarse vuelva a hacerse vuelva a firmarse el acuerdo presupuestario eta

recentralizador usted representa en este momento es el estandarte de el españa

un proyecto político contrario a lo que usted defiende horregatik kritikatzen gaituzue horregatik esaten duzue gu

en otros ámbitos institucionales y como el señor damborenea y el partido popular bien sabe la capacidad para el acuerdo de nuestro grupo parlamentario y del gobierno vasco

a este ámbito institucional únicamente a las relaciones entre el gobierno vasco y los distintos grupos parlamentarios y como al principio

de que tenemos que lograr acuerdos con otros grupos parlamentarios pero lo que no podemos permitir es que haya injerencias de otros ámbitos institucionales para que podamos lograr ese acuerdo parlamentario en el dos mil trece el gobierno vasco presentó

el acuerdo de otros grupos parlamentarios ustedes el partido popular presentó una enmienda a la totalidad y tuvimos que retirar el proyecto de ley de presupuestos

posteriormente tuvimos capacidad y pudimos llegar a un acuerdo transando

este año se les ha ofrecido lo mismo

el año pasado sin embargo no lo han aceptado por qué porque ha habido injerencias de otros ámbitos institucionales en segundo lugar porque ustedes

la estabilidad presupuestaria sin embargo presentan iniciativas como la que recientemente el grupo popular vasco ha presentado

la proposición de ley para considerar derecho subjetivo las ayudas para la conciliación laboral y familiar

perfectamente lo presentan este año y ustedes saben que eso es un ataque frontal

ustedes saben perfectamente que eso es un ataque frontal y que desvirtúa las magnitudes presupuestarias

aquí señor damborenea de lo que el partido nacionalista vasco

un incremento de treinta y seis millónes en inversiones un incremento de un tres coma uno por ciento y nos reivindicaba nos decía que tendríamos que hacer aquí lo que

van a hacer ustedes lo mismo con esta proposición de ley lo mismo que han hecho aquí en madrid van a ustedes a reivindicar y defender que sea derecho subjetivo

si es que ni las tienen no apelen a la coherencia cuando tienen ustedes una contradicción de esta naturaleza en un doble sentido en iniciativas que en otros sitios no defienden y aquí defendiendo la estabilidad hiriendo frontalmente atacando frontalmente a esa estabilidad

a llegar a un acuerdo presupuestario gertatzen dena da hori ez dela zintzoa zuek

gure arteko akordioak lortzea son perfectamente conscientes de que eso es lo que la ciudadanía nos reclama que lleguemos a acuerdos

nos vamos a olvidar de posiciones maximalistas eta bigarren fase horretan urruntzean

eta gainera sinatutako akordioak ez dituzuela betetzen no cumplís la palabra dada

que sí han facilitado que tuvierais presupuestos allí donde estabais

el partido nacionalista vasco y el partido socialista ninguna

tenéis más de una opción para sacar los presupuestos y habéis sido incapaces

la misma distancia entre un proyecto político y el otro la misma distancia para ustedes

un recorrido una trayectoria que el partido nacionalista vasco con voluntad sincera de avanzar de dotar de estabilidad a las instituciones vascas ha recorrido en más de una ocasión

realmente y con sinceridad hori da egia eta horrek

desprestigiar horadar minar nunca

se cree usted que me imagino los datos que le voy a comentar índice gini

europeo eta hor gaude gu europako lurraldeen artean euskadi al nivel de los países

nos comparamos sí con el entorno europeo y esto no nos lleva a relajar nuestros esfuerzos para seguir

en ningún caso relajamos nuestros esfuerzos pero desde luego yo creo que es de recibo y es razonable que todos y es lo mínimos que se le puede exigir a una formación política responsable que todos

que el modelo vasco de desarrollo humano sostenible ha resultado bien que ha dado buenos resultados y que estamos en una situación crítica

pero que ahora alejándonos de la línea que plantea el señor damborenea tenemos que hacer

por fortalecer el gasto social horregatik igotzen dira

gracias presidenta como es habitual la señora gorospe no ha dedicado demasiado tiempo en contestar los argumentos planteados por upyd aunque eso sí ha mostrado síntomas nuevamente de agresividad a la formación que represento en todo caso

vayamos a darles a ustedes las gracias porque en estos dos años de gobierno precisamente los índices relacionados con la precariedad con la desigualdad y con la pobreza hayan crecido porque esta es realidad señora gorospe

me remito las cosas en euskadi están peor desde que ustedes gobiernan hay datos evidentes datos ciertos y datos concretos que así lo demuestran por eso tengo que volver a decirle señora gorospe por mucho que usted

que ustedes ya han fracasado ya han fracasado en sus dos años de gobierno y han fracasado porque no han podido han sabido resolver los problemas fundamentales que padece la ciudadanía vasca y estos son datos hechos son hechos ciertos datos concretos reales se ha incrementado la precariedad se ha incrementado

y se ha incrementado la pobreza desde que ustedes gobiernan este es un hecho cierto por eso vuelvo a reiterar que ustedes ya han fracasado hay dos características fundamentales que caracterizan gobierno la incapacidad y la insensibilidad incapacidad porque no han sabido resolver esos graves problemas que sufren miles de ciudadanos e insensibilidad manifiesta porque nos han presentado un proyecto de presupuestos sin novedades un proyecto de presupuestos que consolida recortes sociales y que no sirve no va a servir ni para crear empleo ni para

apoyar a esos miles de ciudadanos que lo están pasando mal por lo tanto es un hecho que los datos van a peor

me remito por lo tanto nuevamente por eso sus dos características fundamentales de este gobierno son la incapacidad y la insensibilidad

señores del partido nacionalista vasco gobernar no es simplemente cuadrar las cuentas se trata de impulsar reformas también que no recortes

cambiar la realidad cambiar la situación mejorar las cosas no incidir en los mismos errores no incidir en todo lo que se ha venido haciendo durante

dos años que ha sido básicamente nada ni una reforma de calado han planteado y nos plantean como ya ha sido señalado por algún otro portavoz un proyecto presupuestario continuista conservador que sigue la misma línea

y ya sabemos cuáles han sido los resultados por eso yo hablaba también no solamente del fracaso político del gobierno vasco sino del fracaso de ese pacto político que ustedes firmaron con el partido socialista de euskadi fíjense lo que decía el señor lópez hace un año en relación a ese documento que ustedes firmaban que es un documento de gran valía

se trata de un acuerdo que va a tener un gran impacto y se trata de la mejor noticia política del momento y de mucho tiempo

ustedes no están resolviendo los problemas de la ciudadanía no han resuelto ni uno solo de los problemas fundamentales de la ciudadanía las cosas están peor

de ciudadanos si es que incluso el propio partido socialista lo reconocía no hace demasiado tiempo en concreto la semana pasada cuando se debatió una iniciativa de eh bildu en relación al consejero

ustedes lo que decía el propio partido socialista no creo que el señor aburto pueda estar satisfecho de la faena que ha

entendemos que en materia de empleo no se cumple nada de los objetivos trazados por el propio ha mostrado una gran incapacidad señor aburto le decía el señor itxaso nosotros vemos que usted ha estado en funciones todo este

digamos casi vegetativo en materia de empleo finalizaba el portavoz socialista hemos perdido el partido y esta es la realidad el propio partido político que apoya este proyecto de presupuestos y les apoya a ustedes les ha dicho la semana pasada que ustedes han sido incapaces de resolver el problema fundamental que tiene euskadi que es la falta de creación la ausencia de empleo digno estable y de calidad se lo décimos desde upyd pero es que incluso el propio grupo socialista la semana pasada se lo dijo directamente

a confiar en su proyecto presupuestario nosotros cómo vamos a confiar en un gobierno que ya ha fracasado en un gobierno que ya ha mostrado nula capacidad y nula insensibilidad

a los problemas reales de la ciudadanía nosotros no confiamos en absoluto fíjense cuáles enmiendas españolista ha planteado upyd enmiendas que suponen incremento

en más de ciento diez millónes de euros enmiendas que suponen incremento del departamento de desarrollo económico y competitividad en casi noventa millónes de euros incremento en el departamento de salud de más de cuarenta

incremento en el departamento de empleo y políticas sociales de casi cuarenta millónes de euros estas son las propuestas y las enmiendas parciales que hemos planteado porque

era posible articular un proyecto de presupuestos no solamente más social sino un proyecto de presupuestos que también incorporase más inversión para crear empleo digno estable y de calidad

lo hemos demostrado que se podía hacer ese proyecto de presupuestos de todas estas enmiendas parciales incremento de diez millónes de euros para las ayudas de emergencia social que ustedes nuevamente volverán a rechazar incremento de quince millónes de euros para ayudas a la conciliación que ustedes nuevamente volverán a rechazar casi doce millónes de euros más para

treinta millónes de euros más para inversión cinco coma cuatro millónes de euros más para vivienda de alquiler y más de quince millónes de euros más para la

y usted en fin habla de proyecto españolista llámelo como usted quiera pero nuestras enmiendas y nuestro discurso lo que pretenden lo que han pretendido y lo que va a seguir pretendiendo nuestra acción política es mejorar la vida

que viva en euskadi es lo que hemos venido defendiendo

no solamente se han mostrado absolutamente incapaces de resolver

de la ciudadanía vasca sino que muestran una enorme insensibilidad y dan otra vez la espalda a miles de ciudadanos vascos que lo están pasando

señora gorospe no me crea a mí créale al consejero de hacienda y cuando el consejero de hacienda los datos que nos envía a este parlamento nos dice que en el presupuesto de este año el que se está ejecutando en septiembre

y usted coge el presupuesto que nos ha traído este mismo gobierno ahora para el año que viene y tiene los capítulos sexto y séptimo y verá que es menor

resulta que la inversión de este gobierno es inferior

esto es lo que nos han mandado a este parlamento

a lo mejor aquí tenemos que hacernos una pregunta con esto del presupuesto social qué es más social para ustedes un presupuesto

o un presupuesto que disminuya las partidas del paro y de la rgi porque como la prioridad era el empleo

es más social de verdad un presupuesto que destina más dinero a pagar eso

desde luego para nosotros es más social un presupuesto que consigue que esas partidas disminuyan

además pagas sus impuestos y desde luego nos parece mucho más social que alguien tenga un trabajo digno estable

a que esté perpetuamente cobrando me da igual si el paro o la renta de garantía de ingresos para nosotros eso es lo social por eso nosotros desde el minuto uno y no este año también el año pasado

que tenía que destinarse la mayor cantidad posible a la creación y al fomento del empleo y seguimos diciendo lo mismo y seguimos manteniendo lo mismo

eso es obligado como tampoco sería más social el presupuesto de mariano rajoy si destina más dinero al paro está obligado

porque la gente está trabajando en vez de cobrar el paro eso es más social para nosotros

pelín distinto luego usted nos dice por qué no se ha extendido el acuerdo del año pasado hombre

hace dos años el pacto institucional de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones porque eso era bueno para todas las administraciones

nosotros estamos dispuestos a apoyar presupuestos aunque luego nos digan que recortamos incluso cuando no gobernamos o donde no gobernamos dijimos y firmamos el acuerdo que firmamos con ustedes

pero usted es pelín contradictoria porque dos minutos antes de decirnos

no tenemos acuerdo aquí porque en otras instituciones no hay usted decía que en el adn del pnv no del grupo parlamentario estaba el espíritu pactista

siempre y cuando el pnv políticamente interpreta que le interesa ese pacto o no le interesa porque si políticamente decide que ni agua a los demás eso también va en el adn del pnv no del grupo en el adn

porque nuestro pacto el año pasado no fue por cuatro enmiendas ni cinco enmiendas ni tres enmiendas

ejecución de las partidas lo hemos visto en los últimos plenos un plan de industrialización con los mayores ingresos de las mayores recaudaciones que se produzcan no sobre lo que tenemos si no sobre lo que en el futuro venga hablamos de un programa de desarrollo rural del país vasco

del que no hemos vuelto a oír hablar hablamos

hablábamos de esas cosas hablamos de priorizar y destinar incrementos en los gastos de capital dado que ello propicia escenarios de crecimiento económico y ceración de empleo esto de la inversión hablábamos de eso esto no se nos ha ofrecido en los presupuestos que se nos han presentado y luego

pequeñez nosotros presentamos una enmienda a la totalidad con disposición a acordar con el gobierno

porque nos enteramos por la prensa mientras estábamos negociando con el gobierno que se retiraba el presupuesto literalmente digo por comentar si hablamos del de dos mil trece hablamos del de dos mil trece

de los derechos subjetivos o no subjetivos y vamos a hablar de las ayudas a las familias y aquí sí me gustaría una respuesta clarita del partido nacionalista vasco no sé si grupo no sé si adn con adn o sin adn

aquí que el partido popular planteé esto en el congreso de los diputados le tendré que preguntar a usted si renunciamos a esta competencia sí sí sí si renunciamos a esta competencia y digo yo que ya puestos y visto

fomentar y crear puestos de trabajo y contratos que es la mitad

qué me está planteando usted que las competencias que tenemos aquí las llevemos al congreso de los diputados las planteemos así

un poco de coherencia por lo menos un poco y por lo menos en esta materia

de rentas de garantías de ingresos por lo visto nadie sabe que existen en casi todas las comunidades autónomas pero bueno

usted sí sabe que eso es competencia nuestra y usted sabe y no me puede decir que hemos hecho una enmienda a la totalidad

las ayudas a las familias que evidentemente para nuestro grupo sí es prioritario y las ayudas a la conciliación y la vida familiar sí es prioritario figura como partida ampliable en el anexo del presupuesto y eso significa o significaba hasta ahora

que evidentemente no se cortaba el crédito cuando se acababa la partida por eso era crédito ampliable y alguien aquí en este gobierno y en este grupo tan social ha decidido que eso de ampliable era ampliable

y por lo tanto se corta y entonces nos dicen que claro no es que para ser ampliable tiene que ser derecho subjetivo oiga pues muy bien nosotros pensábamos que no de hecho no había hecho falta hacerlo derecho subjetivo hasta la fecha porque era ampliable en el anexo tres de los presupuestos ahora si este gobierno nos dice que tiene que ser derecho subjetivo

como todas como cada una de las seiscientos que hemos presentado más de seiscientos todas son una enmienda a la totalidad si llegamos a un acuerdo

en definitiva todas tienen finalidad de totalidad pero no las presentamos por presentarlas nos dan igual no cuando nosotros planteamos

lo planteamos porque nos parece muy importante o cuando planteamos que se incremente la ayuda a las familias con hijos e hijas y para conciliar la vida familiar y laboral lo planteamos porque nos parece muy importante

es muy importante para nosotros y la podríamos considerar como enmienda a la totalidad para nosotros porque si no llegamos a un acuerdo evidentemente votaríamos a en contra votaríamos en contra pero me preocupa que para ustedes

sea un tema tan importante que lo consideren una enmienda a la totalidad y que no se pueda pactar no sé por qué porque con el pacto que tienen ustedes

o no porque cuál es su preocupación de que se apruebe o no se apruebe esa propuesta que ha hecho el partido popular

será porque la cámara lo quiere y la cámara lo sabe antes de aprobar estos presupuestos ustedes han decidido que eso no se pueda ejecutar el año que viene pero lo deciden hoy aquí partido socialista y partido nacionalista vasco con independencia de lo que apruebe o no este parlamento el año que viene o cuando sea con esa proposición que hemos hecho

que esto eleva el gasto del presupuesto claro todas las enmiendas elevan el gasto del presupuesto en algunas materias otras como hemos presentado nosotros

disminuyen ese gasto en otras partidas y no

para que algunos vividores del euskera en fin trabajen en otra cosa que no hace falta que vivan del erario público

cuantos chiringuitos hay en muchos sitios que no tiene nada que ver con el euskera eso es otra cosa pero lo preocupante del debate de hoy es que al partido nacionalista vasco

tan mal que el partido popular diga que las ayudas a las familias tienen que ser un derecho subjetivo

vividores chiringuitos se nos ocurre seguramente a muchos

a realidad parasitaria que en el euskera y los tienen más cerca quien

señora gorospe yo he planteado un debate y usted se ha quedado en la superficie del mismo se ha quedado en la espuma nosotros le planteábamos

a seguir si quiere por ahí y usted se ha quedado en la espuma en las formas y en el fondo

no me preocupa que usted lleve a lo personal debates que son políticos en todo caso le define a usted no a mí el cómo me defina yo o el cómo me definan yo creo que es algo que puede constatar cualquiera además con las redes sociales y con internet es muy fácil pero usted hablaba de la euskal bidea y hablaba de otras realidades para intentar situarme a mí en esos contextos concretos yo le diré

que en este parlamento yo voté el plan ibarretxe por lo tanto no es una caída del caballo de última hora la que usted me imputa que yo estuve en el plan de lizarra garazi en el acuerdo de lizarra garazi con quien está a su lado

y discutiendo sobre muchas cosas por lo tanto tampoco es una admonición

mi defensa de los derechos de este pueblo tienen que ver con el carácter democrático con lo que quiero que es una democracia con lo que quiero que sea el respeto absoluto de todos los derechos para todas las personas en todo euskal herria no tiene nada más que ver con eso por lo tanto si quiere percutir por ahí lo único que demuestra

a entrar a la profundidad de los temas probablemente es un debate más cómodo probablemente para alguien que acude a los debates y entiéndalo

con una armadura de templario haciendo de guerrera de la fe fededun por supuesto más que a la línea argumental

pueda esperar de este debate soluciones más allá de una especie de suerte de mala esgrima dialéctica que se hace a base de mandobles y no de florete y yo no voy a entrar a ese juego

usted nos habla de la euskal bidea que nos da igual que no es una cuestión de patentes que no es una cuestión de se tiene que venir a no sé qué nuestro o si ustedes llevaban más tiempo que lo único que estamos planteando y también

no es solo con el pnv no es que confiemos hasta la extenuación en ustedes

pero no nosotros necesariamente no nosotras necesariamente que nosotros lo que décimos es que frente a la cerrazón del estado

a incluso realizar unas cuentas mutiladas por una deuda que no hemos generado pero que nos vemos obligados a pagar

que seamos capaces de generar un proceso constituyente propio un camino propio eso es lo que décimos

pero digan si están dispuestos a iniciar ese camino o esperar el siguiente portazo hablaba

ya me acuerdo yo de ese viaje a madrid ya me acuerdo yo de la sensación que le quedó a todos los parlamentarios y parlamentarias que acudimos allí

y nueve años después volvemos a poner las narices para que nos casquen en las mismas con la misma puerta bueno no parece una línea evolutiva no parece una línea de valentía y de osadía pero si esa es la voluntad

pero más allá de eso usted ha señalado que les gustaría contar con más apoyo político con más apoyo social

ha repartido culpas para los diferentes partidos yo voy a jugar limpio no voy a revelar

no porque sean secretos sino porque creo que dejan muy en evidencia cuál fue la voluntad de unos y otros

cuántos esfuerzos hicimos desde euskal herria bildu para intentar aterrizar a lo concreto cuáles eran las dificultades más allá del tren de alta velocidad más allá y cuáles fueron las respuestas le podría hacer hasta el corolario de temas de lo que hablamos algunos nada tenían que ver con presupuestos

lo que sí le digo es que nosotros en todo momento hemos intentado buscar un acuerdo no con ustedes porque sean buenos la ciudadanía vasca ya se está dando

y que era nuestra obligación hacerlo y que quedarnos en el juego de trincheras en el esgrima dialécticos o en los mandobles dialécticos ayudaba muy poco y que si la situación es de emergencia

lo que nos urgía la ciudadanía es que fuéramos capaces de intentar encontrar soluciones conjuntas y eso es lo que hemos intentado hacer y lo que seguimos intentando hacer y la respuesta

desde el primer minuto de esa hora y cuarto que duró la reunión primera y única que hemos tenido fue no se puede tocar nada esa fue

millónes de euros se ha hecho el presupuesto de alto contenido social y el más real de los posibles

qué ley matemática que ley presupuestaria impide

el destino de las partidas por ejemplo para cubrir la renta de garantía de ingresos por ejemplo para cubrir las ayudas de emergencia social por ejemplo para cubrir las ayudas de conciliación

para hacer todos esos movimientos o un fondo por el empleo ninguna es una cuestión de voluntad política y ustedes creen que han ido hasta donde tienen que ir y nosotros les décimos que hasta donde han ido

a la intemperie y ustedes seguramente dirán que más no pueden hacer

significa que no hacen lo suficiente esa es la lectura si quiere de confrontación que realizamos con sus presupuestos

no se trata de que nosotros estemos diciendo hoy esto porque hayamos visto que la ciudadanía nos reclama acuerdos no la ciudadanía nos podrá reclamar acuerdos con el pnv o con quien sea y eso no es lo que más nos preocupa es un indicador

y nos reclama respuestas y nos reclama que nos dejemos a veces de nuestra

diferencia política para ver en qué cosas concretas nos podemos poner de acuerdo y su respuesta ante eso es decirnos que no somos sinceros

tan infalible que les permite albergar esperanzas todavía en que rajoy sí es sincero

la realidad es que no se mueva nada bien si eso es todo lo que tienen que decir frente a nuestra propuesta

de intentar hacer algo mejor para la ciudadanía se dejan bastante en evidencia

porque si quieren testar la sinceridad intenten llegar a acuerdos intenten comprometer nuestra palabra y nuestra firma en algo porque usted nos habla de gipuzkoa para explicar no sé qué voluntad de incumplimiento por nuestra parte no somos de fiar no somos sinceros sería la conclusión hasta donde yo sé igual tiene usted otra información en octubre se aprobó una norma foral que pretendía

minoritaria de las juntas de gipuzkoa es decir pnv psoe y pp de común acuerdo

a nosotros de parejas sucesivas o de monogamias sucesivas lo vuestro son los tríos parece más pero como decía ahí había un acuerdo para la promoción económica ese acuerdo para la promoción económica se cumplió punto por punto en la propuesta de presupuestos punto por punto

no hacemos de esto un mundo no les llamamos mentirosos ni les llamamos gente de no fiar lo que le décimos es que más allá de sus diferencias y de las que tengamos con el partido socialista y con otros

y sobre todo todas esas decenas de miles de personas que lo están pasando francamente mal

nos vienen con la misma no es tampoco nuestra pretensión neutralizar al pnv usted ha sacado aquí una definición que no sé

que el pnv se neutraliza en función de lo que hace que la gente que ahora señala que no confía demasiado en la acción de gobierno no son todos votantes de eh bildu será ciudadanía en general

que señala que ustedes no están dando respuesta a sus problemas ustedes se neutralizan a sí mismos no haciendo nada o siguiendo esperando de madrid lo que no va a darles nunca se lo he dicho antes todas estas enmiendas fueron aprobadas por el parlamento vasco todas

todas hacen alusión a los temas sociales que he comentado antes ustedes y ustedes

de estas enmiendas para cumplir lo que este parlamento ha dicho no digo para dar gusto a euskal herria bildu para cumplir lo que este parlamento ha dicho

aquí se habla mucho del respeto que tenemos que tener a esta cámara se nos reprocha en muchas ocasiones que faltamos al respeto con algunas actuaciones por parte de eh bildu a esta cámara no creo que haya mayor falta de respeto

como no me parece tampoco la mayor muestra de respeto parlamentario no facilitar que se reúna una comisión para tratar el asunto el problema de unos trabajadores los de bizala que llevan dos meses y medio sin trabajar y que porque

van a tener que estar sin cobrar estas vacaciones también besterik ez eskerrik asko matute jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

se refiere y nos enseña las proposiciones no de ley que se han aprobado en esta cámara pues problema tendría quien tuviera intención de votarlas porque es que han presentado una proposición

si es que proponen dos iniciativas para lo mismo en sentido contrario por vías distintas pues están buenos qué van a hacer qué harían ustedes

superficialidad es algo absolutamente recurrente en usted

en muy alta estima señor maneiro y le volví a decir el problema

señor matute disculpe señor matute se tiene en muy alta estima

no lo encuentro digo dónde estará cuando ha dicho eso digo a ver en qué profundidades entra

nosotros el modelo vasco usted estaba hablando de que cada vez había personas que están en peor situación y es verdad es verdad pero

adoptando un montón de medidas a diferencia de otros sitios que están aliviando que están aliviando y se van a seguir adoptando medidas en ese sentido para aliviar en la medida de lo posible la situación en la que algunas personas están viviendo

es donde a los pensionistas se les compensa sus pensiones en euskadi aquí hay ayudas para el copago farmacéutico para las personas que tienen menos recursos aquí se dan ayudas para la conciliación familiar y laboral aquí se tiene una rgi bastante más alta que en otros sitios aquí se ha incrementado en el presupuesto

somos referencia y tenemos que seguir moviéndonos en esta vía usted señor matute decía que hablamos de un choque de modelos

y el choque de actitudes actitudes el respetar y apoyar al colaborador y el que ningunea al que pretende colaborar si no es por la vía

antes preguntaba usted cuál era la apuesta del gobierno a ver si la apuesta era por la nada y

lo más social es un modelo que conjuga que conjuga la apuesta por el bienestar social el fortalecer las ayudas sociales

serias para reactivar y para incentivar la economía y generar empleo que es lo que tenemos que conseguir ayudar al tejido empresarial para que se pueda ir generando empleo el sistema más social es

no el que contrapone todas las intervenciones batzordean esan genuen bezala

posible izan daite desde luego esa es la voluntad del partido nacionalista la voluntad y el deseo como manifestamos en comisión en política y en la gestión pública a veces se logran acuerdos y otras veces no se logran acuerdos pero nosotros nosotras estamos siempre dispuestas a hablar a continuar manteniendo relaciones a continuar

avanzar para progresar y para lograr la estabilidad y el progreso de euskadi para que todas las personas que viven en este país

bien para los socialistas la estabilidad presupuestaria no supone un valor en sí mismo es verdad desde luego que es positivo disponer de un presupuesto actualizado

si este proyecto responde adecuadamente a las necesidades de la sociedad en ese momento concreto de lo contrario es mejor una prórroga de las cuentas del año anterior

con el primer proyecto de presupuestos que presentó este gobierno en el dos mil trece

los socialistas lo que no practicamos es el principio de la estabilidad presupuestaria a conveniencia es decir que es imprescindible cuando a mí me viene bien

en las principales instituciones vascas este grupo parlamentario ha cumplido con su responsabilidad ante la ciudadanía vasca y con el compromiso que asumió de facilitar

si el año que viene es un año electoral o no solo hemos mirado si este proyecto reunía unas condiciones mínimas lo hemos dicho muchas veces y lo repito ahora este no es el presupuesto que hubiera elaborado un gobierno socialista es un proyecto

y le falta ambición para impulsar la economía productiva y el empleo le faltan apuestas claras prioridades sostenidas con recursos y le sobra rutina

este proyecto sin embargo no se puede decir que sea un presupuesto peor que el del dos mil catorce

de no recorte de los servicios públicos y mantenimiento del sistema de protección social con especial protección

al contrario si este presupuesto es mejor que el anterior se debe fundamentalmente a la insistencia del partido socialista y si dispone de más recursos para atender esas necesidades no es por una mejoría de la situación económica

sino porque ha tenido efecto la reforma fiscal que aprobamos el año pasado sí esa reforma que los socialistas venimos reclamando desde el dos mil nueve y que se le negó a este país por puro cálculo partidista y sinceramente no queríamos que la administración de los ingresos adicionales que este año tenemos en euskadi gracias a esa reforma fiscal quedará exclusivamente en las manos de un gobierno

la salida de esta crisis y no busquen ustedes tres pies al gato el compromiso de los socialistas no es con el pnv ni con el gobierno vasco es con las sociedad vasca y el único eje que defendemos y en el que siempre vamos a estar es el de la igualdad y la solidaridad

hemos facilitado la aprobación de estos presupuestos porque hemos logrado que se incorporen al menos ciento cincuenta millónes de los recursos adicionales obtenidos por la reforma fiscal

a políticas al servicio de la ciudadanía y porque hemos conseguido reforzar esa cantidad con treinta y cinco millónes más para reforzar actuaciones y programas concretos en esa dirección en total ciento ochenta y cinco millónes para luchar con más decisión contra el desempleo en favor de la reactivación económica y de la innovación para mejorar la atención de quienes están sufriendo los embates de la crisis

que no pueden ni siquiera pagarse la electricidad para no dar pasos atrás en la cohesión social para mantener intactos los servicios públicos de los que todos nos beneficiamos

innovadores es decir en términos muy parecidos al del año pasado algún partido político

malos malísimos lo que no se acompaña mucho con que el año pasado fueran parecidos y parece que la única diferencia está en unos pocos millónes de euros que no han dado para algún ayuntamiento en cualquier caso algún partido político ha hecho referencia también a que esto lo hemos votado simplemente por intereses particulares para favorecer algunos ayuntamientos socialistas

o de legutiano o de pasaia donde que yo sepa no gobierno el partido socialista y para las que hay

que euskadi tenga en el dos mil quince unos presupuestos por responsabilidad y por compromiso con esta sociedad y lo hemos hecho como ustedes han visto con el respaldo justo y suficiente porque por nuestra parte este gobierno tiene solo el apoyo justo para hacer lo que figura en estas cuentas